sí muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor lehendakari buenos días hemos debatido unas cuantas ocasiones todo lo que tiene que ver con los asuntos relacionados con epsilon e hiriko y las diferentes decisiones políticas que se tomaron en relación a esta cuestión se decidió la puesta en marcha a iniciativa de upyd de una comisión de investigación para detectar en última instancia y yo creo que esto era lo más importante las responsabilidades políticas que hubieran podido existir en relación a esta cuestión para saber efectivamente dónde están las responsabilidades políticas de este fiasco monumental que tuvo como consecuencia

nosotros entendemos que cuando se crea una comisión de investigación y se localizan una serie de concretas responsabilidades políticas pues

una serie de consecuencias ya digo que tal como expliqué en el último pleno de control no es mi intención

y de lo que ya se aprobó lo cierto es que finalmente se aprueba un dictamen que dice lo que dice aprobado por la mayoría de este parlamento únicamente el partido nacionalista vasco votó en contra de lo que dice este dictamen en nuestra opinión es evidente que

recogidas tienen que tener consecuencias políticas esta es nuestra opinión y estamos a la espera de qué es exactamente lo que dicen los demás grupos

planteamos o si finalmente van a mirar para otro lado o van a proponer otra serie de medidas que nosotros consideramos por lo que hemos leído en alguna

creo que tenemos que trasladar a la ciudadanía vasca que cuando hay determinados representantes políticos que toman decisiones equivocadas

equivocadas se recogen finalmente en un dictamen aprobado por una comisión de investigación ya digo que esto debe tener consecuencias políticas y hay que lanzar el mensaje

estas personas responsables no pueden seguir trabajando para la administración correspondiente y por lo tanto nosotros lo que proponemos digamos que es una moción lo reconocemos

ese mensaje a la ciudadanía vasca lo cierto es que el dictamen de la comisión especial de investigación fue finalmente aprobado por el pleno del parlamento vasco el pasado día dos de octubre y en el capítulo referido a las responsabilidades políticas referidas a epsilon se señalan responsabilidades políticas

de los siguientes órganos se dice las personas que formaban parte del consejo vasco de promoción económica que en su sesión número once de veintiocho de noviembre de dos mil siete declararon a lo presentado por epsilon euskadi scincuenta como proyecto estratégico

de fondos estratégicos y las personas que formaban parte del consejo de administración de la sociedad parque tecnológico de álava sa y que en su decisión

de participación en ejecuciones hipotecarias manifestaron su conformidad con las referidas operaciones ratificando en consecuencia las actuaciones realizadas por el presidente del consejo de administración

de la red de parques tecnológicos de euskadi qué es lo que nosotros proponemos que diga este parlamento al gobierno y en concreto al lehendakari pedimos que este parlamento

a las personas que el dictamen aprobado considera responsables políticos es decir aquellas personas que formaban parte de esos consejos en esas fechas determinadas y que efectivamente y finalmente nombramos con nombres y apellidos en nuestra propia moción y hablamos de la señora arantxa tapia consejera de desarrollo económico y competitividad

de justicia hablamos del señor juan miguel bilbao viceconsejero de hacienda hablamos del señor lacalle director de presupuestos hablamos del señor rodrigo garcía director de coordinación de seguridad y hablamos del señor alejandro lópez cárcamo director

los nombres y los apellidos de estas personas no aparecen en el dictamen finalmente aprobado pero es obvio que estas personas formaban parte de esos consejos políticos y por lo tanto lo que este parlamento ha dicho muy claramente y por clara mayoría es que estas personas entre otras tienen

y cuando hay determinadas personas que toman determinadas decisiones y provocan el fiasco monumental que se provocó yo creo que lo lógico y lo razonable es que

se las destituya se las cese de sus cargos ya digo hubo una comisión de investigación

los trabajos correspondientes durante unos cuantos meses en esa comisión de investigación los diferentes grupos pudieron presentar las alegaciones

consideraron pero en todo caso finalmente se aprobó un dictamen que nosotros consideramos que es lo suficientemente claro como para que este parlamento apoye la moción

ya digo cuando hay responsabilidades políticas entendemos nosotros que tiene que haber consecuencias políticas el dictamen no dice que haya habido corrupción

el dictamen no dice algunas otras cosas que a nosotros nos hubiera gustado que hubiera podido decir no dice todo lo que a nosotros nos gustaría ni dice todo lo que nosotros pensamos que quedó claro a través de las comparecencias que hubo en esa comisión de investigación las alegaciones planteadas por upyd

pero sí se aprobó este dictamen y se dijo que estas personas eran responsables políticos de este derroche de dinero público y de estas decisiones profundamente acertadas ya digo en nuestra opinión esto tiene que tener consecuencias políticas se nos decía la semana pasada desde el partido nacionalista vasco que no se puede judicializar

actividad política no lo pretendemos pero sí que décimos que puesto que se señalan responsabilidades políticas tiene que haber consecuencias políticas

la destitución de sus cargos de todas estas personas yo espero que el parlamento esté a la altura de las circunstancias y lance un mensaje claro a la ciudadanía ya digo no dice el dictamen que haya habido corrupción

a la justicia de manera inmediata pero sí señala una serie de responsabilidades políticas es por esto que nosotros presentamos esta moción

personas y por lo tanto el dictamen finalmente haya servido para algo si no da la sensación que estas comisiones de investigación y estos dictámenes que

y no tienen consecuencias políticas espero que al menos los grupos que votaron a favor del dictamen voten a favor de la moción planteada por upyd muchas gracias

egun on guztioi presidente andrea el señor maneiro como acaba de explicar

a que destituya a distintos cargos de su gobierno

al respecto el grupo socialista tiene una postura política clara que es coherente

respecto al dictamen de la comisión de investigación dictamen por cierto a cuya existencia hemos contribuido de forma decisiva y de este dictamen a los socialistas nos parece fundamental que se cumplan tres cosas una que se atiendan las conclusiones que recoge también

y por último que se apliquen sus recomendaciones íntegramente y en su totalidad en definitiva

y que esclarece asuntos de mucha importancia porque estamos ante errores muy importantes el dictamen concluye que hay responsabilidad política por haber decidido actuaciones perjudiciales para los fondos públicos basándose

no habituales como en el caso de epsilon con la cesión de rango hipotecario en el parque tecnológico de álava y tanto en epsilon como en hiriko arriesgados por la falta de solidez del proyecto y por la enorme desproporción entre la abundancia de fondos públicos

así que es indudable que ha habido una mala gestión por parte de responsables políticos y eso es lo que dice el dictamen también es cierto que en gran medida

que desde la actividad privada han contribuido a hundir esos proyectos en algunos casos cometiendo incluso delitos como recoge la sentencia de concurso de acreedores culpable para epsilon finalmente el dictamen establece claramente dónde están todas esas responsabilidades

que esas situaciones se repitan hasta aquí lo que tenemos en las manos es un buen trabajo

ya en el mes de julio en el cierre de la comisión de investigación yo dije que a partir de ese momento era el ejecutivo

y tomar sus decisiones y nosotros mantenemos la línea de coherencia

a las actuaciones en la comisión y en sus consecuencias por eso

exigimos al gobierno vasco que cumpla las condiciones del dictamen sobre las ayudas públicas recibidas por las empresas epsilon e hiriko y que aplique también lo estipulado en el código ético que rige la conducta de sus miembros de los miembros de este gobierno

ante la reacción del lehendakari quien ha dicho que respeta

pero que no las comparte porque en su opinión se trata de un informe político elaborado y aprobado por la oposición que ha concluido con una sentencia y vuelvo a citar una sentencia política deseada

en qué estaría pensando una comisión parlamentaria necesariamente formada por representantes políticos al hacer la labor política para la que les han elegido los ciudadanos cuando han asignado responsabilidades políticas a responsables políticos por su mala gestión

en aclarar el mal uso del poder público en definitiva en hacer política en el mejor sentido de la palabra tampoco es admisible que el lehendakari dijera

eso es faltar al respeto a esta cámara cuando todos los grupos políticos excepto el pnv lo que supone el sesenta y cinco por ciento

de este parlamento aprueban un dictamen en el que se asignan a miembros del gobierno responsabilidades políticas relacionadas con la mala gestión de asuntos importantes con riesgo además para cantidades importantes de fondos públicos cuando esto sucede el pnv

y replica acusando a todo el mundo de estar en su contra entonces deberíamos preguntarnos cuando en muchas ocasiones una mayoría amplia vota con el pnv es también una confabulación de la oposición solo que en este caso sería a favor claro pues ni lo uno

yo ya entiendo que es un trago para ustedes pero no es admisible que el lehendakari denigre las decisiones de este parlamento y que además lo haga por interés partidario por eso tiene un más sentido a la exigencia del grupo socialista de que el gobierno aplique el código ético

todos sus miembros el gobierno está obligado a activar los mecanismos de ese código para analizar las conclusiones del dictamen sin que eso prejuzgue a las conclusiones de la comisión de ética que el propio código prevé fíjense que en ese código se afirma que está dirigido

ética y la actuación eficiente de los cargos públicos y asimilados que forman parte de la alta dirección ejecutiva del gobierno vasco y dice también que si se acredita un incumplimiento un sistema interno de seguimiento que puede terminar con el cese de la persona en el puesto de trabajo que ocupe o en su caso con la formulación de recomendaciones a los órganos competentes para que se corrijan las desviaciones producidas así que el gobierno ya sabe lo que tiene hacer y nosotros le exigimos que se ponga a ello

en cualquier caso otra cosa ha quedado clara este parlamento ha signado responsabilidades políticas relacionadas con la mala gestión de asuntos públicos

de muchos millónes de euros y lo que nadie puede evitar es la evidencia

el partido nacionalista vasco no es el buen gestor de los asuntos públicos que dice ser para terminar sí me parece oportuno recordar que no hay indicios de que ninguno de los responsables políticos se haya quedado con dinero lo que

operaciones arriesgadas con demasiada alegría por ayudar a proyectos que no tenían una base sólida y eso es lo que tendrá que valorar el gobierno vasco en cualquier caso a los socialistas nos importa mucho que las decisiones que se tomen sirvan para evitar que se vuelvan a producir casos como los de epsilon e hiriko y finalmente

resultase alguna responsabilidad penal la actuación del gobierno debería ser fulminante y por supuesto nosotros lo exigiríamos

creo que podríamos encontrarnos todos en mi enmienda y exigir así al gobierno que actúe en cualquier caso anuncio por coherencia con todo lo que hemos defendido

que votaremos en contra de la moción del señor maneiro porque creemos que la vía es la que expresamos

precisamente porque el primero no se cerró debidamente tal y como pedíamos algunos de los grupos soilik diru publikoarekin finantzatu

nahasten dituen kasu bat nosotros y nosotras lo hemos tenido siempre claro existen responsabilidades políticas

y de continuar así existirán responsabilidades políticas en el futuro en un caso de corrupción malas prácticas clientelismo y amiguismo de partido como ha sido el caso

a otras personas que en el pasado fueron corresponsables de las decisiones políticas tomadas

ya que entendemos que también esas decisiones les afectan en el presente y en el futuro si se diese la situación de que volviesen a las instituciones públicas con nuevos cargos por lo que creemos mejor dejar clara la responsabilidad inmediata de todos ellos en esta cuestión para imposibilitar con ello que queden libres de sus decisiones pasadas fijando así un muro de contención para el futuro gure iritzia argi da

como decía nuestra postura es clara no estamos hablando en el caso epsilon e hiriko de hechos aislados sino de una connivencia clara entre el poder político y una élite empresarial vasca cercana al poder por ello hay que eliminar de raíz y para siempre de los cargos de responsabilidad a aquellas personas que aceptaron poner por encima de los intereses de la ciudadanía los intereses privados de los empresarios existen responsabilidades políticas y hay gente que se debe asumir su participación en esos casos siendo esto así

a la hora de plantear la iniciativa este tema es lo suficientemente importante como para no perder la votación

no va a votar porque así lo ha dicho en numerosas ocasiones que se identifiquen con nombres y apellidos a las personas con responsabilidad política en este caso de trato de favor esta es una votación perdida de antemano es todo un ejemplo de irresponsabilidad política

le daremos nuestra abstención no por devolverle la pelota y pagarle con la misma moneda con la que él paga siempre las iniciativas y el trabajo de eh bildu

para poder permitirnos perder esta votación y por otro lado

y por coherencia con las anteriores votaciones en relación a este tema nosotros y nosotras situamos la responsabilidad política en todas las personas que aparecen en nuestra enmienda a la totalidad

que aporta upyd y las que añadimos nosotros al dictamen horrela bozkatu dugu beti talde mistoak txostenean aurkeztu zituen zuzenketen alde

nos abstendremos también en la propuesta del partido socialista de euskadi

primero porque no se habla de personas concretas en las conclusiones del dictamen

única de ese grupo y lo que obliga a presentar iniciativas como estas y a perder votaciones para aclarar responsabilidades aquella decisión que tomó el pse ayuda a que sea en última instancia la decisión del gobierno la que prevalezca

de alguno de sus miembros eso no es aceptable ni respeta el espíritu del dictamen

nos abstendremos porque desde euskal herria bildu ya hablamos más de una vez cuando hubo cerrado la comisión de investigación sobre el código ético pero en aquel momento una vez más nos quedamos solos en la oposición y ahora al igual que sucedió con las patentes el pse

pero lo hace desvirtuando la petición inicial y desnaturalizando lo que debería ser esa reclamación

la responsabilidad en ninguna persona concreta y lanzándoles

por si no se acuerdan erkoreka haciendo de abogado defensor de las personas señaladas en el dictamen ya dijo que no se aplicaría el código ético a estas personas

la contestación previa del gobierno y la contestación previa fue no así las cosas creemos que el presentar esta iniciativa para perder solo favorece al gobierno

casos más graves de amiguismo clientelismo e irresponsabilidad política para con la ciudadanía la ciudadanía no va a entender el resultado e incluso entenderá que al final de todo este camino aquí no ha habido ninguna responsabilidad

actual y el gran fiasco de aquellos que no solo creemos que en este caso es un caso evidente de corrupción sino que hemos trabajado para que toda la verdad

lehendakari miembros del gobierno señor maneiro usted

sobre esta cuestión y upyd nos pone sobre la mesa un tema que efectivamente ya está debatido que ya fue dictaminado por este parlamento y que ahora está residenciado en la responsabilidad de hacer del gobierno

de estas cuestiones ya hemos hablado con todos los respetos señor maneiro esta iniciativa no la entiendo esta iniciativa no aporta nada

hubiera tenido que tramitarla por reiterativa pero siempre respeto su decisión por mayor por mejor criterio en la aplicación del reglamento este tema ya estaba debatido pero efectivamente usted lo ha visto

no aporta nada no aporta nada y puede tener usted razón en las cuestiones que plantea pero este tema ya ha sido objeto de un acuerdo parlamentario que obliga al gobierno a actuar

actuaciones de organismos públicos y que fijó responsabilidades políticas por las decisiones en torno a los fiascos empresariales e hiriko señor maneiro ya hemos tenido una iniciativa previa aprobada una comisión de investigación y un dictamen aprobado este trabajo esta cerrado en vía parlamentaria en cuanto a pronunciamientos de la cámara ahora cabe el control de la actuación del ejecutivo su interpelación el otro día estuvo bien planteada como lo estarán otras interpelaciones

para ver y conocer cómo cumple con las cuestiones a las que el dictamen de epsilon e hiriko le obliga a este gobierno pero esta moción señor maneiro no aporta nada no estamos de acuerdo con su estrategia en relación con este cuestión

que a firmes no nos ganan pero señor maneiro hay que buscar la eficacia no el efectismo eficaz fue el acuerdo parlamentario del pasado día tres de octubre que nos obligará y nos permitirá controlar al gobierno de verdad

no tiene apoyos suficientes y además ha sido enmendada busca el efectismo y esa estrategia a nosotros no nos gusta usted se ha equivocado señor maneiro

vamos a abstenernos en su iniciativa compartimos que han existido responsabilidades políticas ya lo hemos dicho con nombres y apellidos pero este tema

en una moción rebajaría el acuerdo parlamentario obtenido en una comisión especial de investigación como usted lo ha dicho era obvio usted mismo ha empleado esa palabra supongo que el parlamento esa

al gobierno en relación con la comunicación de los acuerdos de esta cámara así que el reloj ha empezado a correr

que este parlamento le ha conferido como también supongo que se habrán enviado las certificaciones a los tribunales de cuentas vasco y del reino en relación

informes muy importantes para seguir trabajando sobre estas cuestiones en el parlamento vasco y dilucidar muchas de las cuestiones todavía oscuras en relación con los fiascos de las empresas epsilon e hiriko el seguimiento de estas cuestiones es nuestra tarea tras la aprobación del dictamen y el cumplimiento de sus obligaciones

si el gobierno no hace nada se lo demandaremos y haremos ver que no cumple con los mandatos parlamentarios y que falta al respeto a este parlamento

usted y yo firmando una iniciativa y la cámara aprobando esa iniciativa y después el dictamen de la comisión de investigación

del reloj que tiene ahora el gobierno el tema fundamental es que el gobierno del pnv falló

tomaron decisiones desacertadas en relación con la aplicación del dinero público esperemos que ahora el gobierno vasco no falle a la hora de asumir responsabilidades y reformar actuaciones y procedimientos incorrectos

que un fanático es alguien que no quiere cambiar de opinión pero sobre todo no quiere cambiar de tema podría pensarse señor maneiro que usted es un alumno aventajado y entiéndame exclusivamente desde la vertiente

toda esta legislatura pienso que usted en su anterior vida debió ser su inspiración

su método de coger un tema machacarlo hasta el final

es más propio de un torturador ideológico que de un parlamentario no solo eso repetida una y mil veces la misma idea termina por integrarla ya no en cerebros desprevenidos no

de trolas ametralladas no se queda usted satisfecho con proponer

donde el éxito es más limitado precisamente porque se trata de indagar en aspectos desconocidos e innovar algo muy difícil de hacer y de lo que usted tan ajeno vive

no se queda usted satisfecho en interpelar al lehendakari solicitando el cese de personas cuyos nombres no aparecen democráticamente en el informe final

de que no cesará a las personas que usted con su dedo de señalar subjetivamente señaló hoy pide al parlamento que le apoye en su obsesión propagandística

no voy a reiterar las palabras del lehendakari que ahí están y toda la cámara escuchó pero sí le voy a decir que hoy ha llegado demasiado lejos en sus obsesiones propagandísticas desde su unicidad parlamentaria independientemente de que algún iluso pueda considerar su actuación meritoria

son conclusiones de una comisión de investigación creada solo para dañar sin más razones que el fracaso parcial de dos proyectos de investigación y la posibilidad de dañar a personas que ocuparon y hoy también ocupan cargos públicos y de dañar al gobierno al lehendakari y al pnv

aspectos que estoy convencido le importan una higa en resumidas cuentas

que en las conclusiones de la comisión de investigación aparecen como motores de responsabilidad política son dos la decisión de la comisión de promoción económica de euskadi y la decisión de cambio de rango de crédito del parque tecnológico de araba respecto a la primera le he dicho hasta la saciedad y usted todavía no lo ha replicado

hecho por expertos que el veintiocho de noviembre del dos mil siete pusieron encima de la mesa de un consejo

arantxa tapia que ni fue que delegó el voto pues bien en aquella reunión se vieron otros proyectos

cuatro millónes ochocientos noventa y cuatro mil para desarrollo de ancho automático de alta velocidad

un millón setecientos cuarenta y dos mil para fabricar piezas del sector petroquímico grupo sapa tres millónes setenta y cuatro mil para un centro de diagnosis de transmisiones ulma cooperativa dos millónes novecientos sesenta y cinco mil para el sector piping

cuatro millónes seiscientos treinta y cinco mil para la construcción de nueva gama de piezas de aerogeneradores

cero euros aquel día se desestimó uno este último

lo que supone que responsabilizamos a no sé cuantas personas de haber aprobado un proyecto que tampoco es fracaso total que ahí están las instalaciones y el know how y que supone el dieciséis por ciento de lo aprobado

que transcurrido el tiempo ha resultado exitoso o no qué está bien hecho en el ochenta y cuatro por ciento de la decisión que no se hizo en el dieciséis por ciento

ni aquí que otorgaron tres millónes de euros ni en madrid que por similar método otorgaron once se actuó con incorrección pero aquí sí por qué en madrid no qué hicieron mal los miembros del consejo de promoción económica me puede decir qué hicieron mal qué chapuza organizaron qué prevaricación qué fraude qué corruptela qué niño muerto en cuanto a la segunda decisión

pretender el cese de altos cargos esa duele más si cabe

que le remitió su asesor jurídico asesor al que por cierto pagaba para que le asesorara y vuelvo a repetirle ese documento en que le remite el formato de contrato a suscribir

se ha dado por no enterado y todavía no me ha contestado a lo que le dije el pasado día por qué no lo cita por qué el informe no cita el documento pero todavía es más grave el tribunal vasco de cuentas por dos veces una por unanimidad en noviembre de dos mil trece y otra por mayoría

sigo esperando su contestación a por qué no lo citan en el informe de la comisión por qué votó usted que en ese documento

después de oído esto que es cierto y verificable qué corruptela cometieron los miembros del consejo del parque en cuánto se enriquecieron qué hicieron que su asesor jurídico dijera que no hicieran qué hicieron que el tribunal vasco de cuentas públicas haya dicho

si unos toman una decisión entre muchas más avalada por expertos de aquí y de madrid si otros toman decisiones avaladas jurídica y administrativamente por el máximo organismo fiscalizador de este país a qué viene pedir sus ceses qué hicieron mal

le llevo a lo que dije hace quince días porque no estoy para repetirme sasi egietan eta egi faltsuetan oinarrituta gezur berri bat egiten denean

cualquier actividad que no asiste a comisiones más que cuando se trata de seguir embarrando

con el concierto con el estatuto con las transferencias pero no se acerca a ninguna comisión que se dedique a construir a debatir no sé

ni una alegación a ningún plan sobre todo si se presenta en comisión que como hay menos público y menos cámaras según usted lo único que le interesa a la ciudadanía es cómo se mueve usted mismo en el barro de sus corruptelas inventadas coge un tema lo manosea lo pudre y luego como

lo hurga para buscar notoriedad a base de laminar instituciones y personas conmigo y con nuestro grupo no cuente nosotros hemos venido aquí a construir

y luego vota y suscribe documentos que usted sabe que ocultan verdades comprobables y eso no es decir la verdad y saber que no se dice la verdad

es prevaricar no solo no le vamos a apoyar en su intento desestabilizador sino que venimos a decirle al lehendakari que cuenta con nuestro apoyo

son responsables sensatas honradas y que lo que hicieron

una mentira con apariencia de verdad por votada que sea nunca debería haber llegado aquí y menos nunca debe ser un argumento para castigar a nadie como dijo napoleón el mal de la calumnia es semejante a la mancha de aceite

y es que el daño ya está hecho señor maneiro y eso no es conclusión del grupo es conclusión solo mía eso yo no lo voy a olvidar muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

porque acompañadas de otras palabras de otros portavoces del grupo nacionalistas vascos e incluso de algunas intervenciones del propio lehendakari en distintos plenos de control pues

gobierno nacionalista del partido nacionalista vasco y lo digo con toda humildad pero están

ustedes más enfadados y más nerviosos y es una cosa evidente y a los hechos me remito y a la forma que tienen ustedes de contestar y de argumentar se les ve cada vez más crispados relájense relájense porque

veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas en los próximos meses y como se va a evidenciar una cosa evidente que

el señor tellería sino que lo que pretende básicamente upyd es acabar con la mentira en la acción política acabar con la mala gestión acabar con el derroche de dinero público acabar con la impunidad de algunos acabar con las corruptelas que asisten a cargos importantes del partido nacionalista vasco y acabar con todas las corrupciones políticas relájense porque un servidor va a seguir estando donde tiene que estar lo reconozco señor tellería soy persistente peleón y trato de defender los principios en los que creo hasta el final y yo

no hago más que recordar qué es lo que dice el dictamen que fue aprobado por esta cámara y el dictamen dice exactamente

respecto a la repetición de los temas señor tellería es radicalmente falso nunca hubo en esta cámara un parlamentario que trajera a debate tantos temas diversos en tan poco tiempo apenas cinco años y nunca hubo un parlamentario que asistiera a tantas comisiones en apenas cinco años y que interviniera tantas veces en tantas comisiones

repase la hemeroteca yo en todo caso no hago más que trabajar para lo que me pagan que es hacer la labor de oposición a este gobierno como

al gobierno del señor lópez dice el señor reyes que el gobierno vasco

ya ha dicho que no piensan hacer nada y que por lo tanto lo que dice este dictamen no lo va a atender

durante esos meses en esa comisión de investigación finalmente

ningún tipo de repercusión política y nosotros pensamos que debe tener repercusión política aplicar el código ético o pedir al gobierno que aplique el código ético en nuestra opinión es absolutamente insuficiente porque además y si no se aplica qué

o volver a traer una interpelación y volver a instar al gobierno vasco a hacer lo que debe hacer decía el señor reyes que casos como este no deben repetirse

así sin más pues lógicamente lo razonable es pensar que pueden repetirse

proponemos una moción que es exigente que es contundente aquellos responsables políticos que llevaron a cabo determinadas decisiones y que supusieron

para los ciudadanos vascos pues no pueden estar contratadas por este gobierno ni trabajar en la administración me parece que es lo razonable y lo exigible

el señor carmelo barrio cuando dice que cree que efectivamente puedo tener razón usted dice puede que tenga usted razón pero no aporta nada en fin en qué quedamos tenemos razón o no tenemos razón y a continuación dice que un servidor se ha equivocado cuando acaba de decir

en lo que planteo y señala que este es un asunto cerrado es un asunto cerrado porque hay determinados temas que ustedes quieren cerrarlos antes de tiempo por qué es muy sencillo de entender señor carmelo barrio porque ustedes tres se necesitan en el futuro y tienen que pactar nuevas cosas en el futuro y por lo tanto

ni el partido socialista de euskadi pueden incomodar demasiado al partido nacionalista vasco porque luego los necesitan aquí o allá para determinados pactos es por esto

upyd porque nosotros tenemos las manos libres y podemos presentar este tipo de mociones ustedes pueden llegar a elaborar ese dictamen y votar a favor

como en tantos otros temas que hemos visto durante estos años que afectan claramente al partido nacionalista vasco en fin termino ya digo hay una comisión ha habido un dictamen este dictamen recoge una serie de conclusiones de recomendaciones y de responsabilidades políticas aunque no aparezcan los nombres y los apellidos se responsabiliza a estas personas

unas determinadas actuaciones que fueron absolutamente incorrectas y que provocaron la pérdida de millónes de euros se trata por lo tanto de que esto tenga

en nuestra opinión personas que llevan a cabo y toman determinadas decisiones que suponen un desfalco de dinero público no pueden ser consideradas personas sensatas
o ejemplares como piensa el señor tellería de ahí maneiro jauna sí de ahí nuestra moción una moción que se presenta para ganar como todas las que presenta upyd gracias eskerrik asko

señor maneiro es fácil de resumir el asunto de hoy cada institución tiene su responsabilidad el parlamento ha cumplido muy bien con la suya y el gobierno tiene ahora que actuar y tiene el instrumento

si se hubiera querido que actuara el parlamento a través de su dictamen pidiendo el cese de estas personas

como bildu podían haberlo puesto y no lo han inscrito

al borrador de dictamen antes de aprobarlo no está recogido no está

ni en las de bildu que se pida que el gobierno cese a esas personas por lo tanto están

el camino que el partido socialista cree razonable y adecuado

actual activando un instrumento que tiene que es el código ético y

en su tejado como corresponde lo que ocurre

la petición de cese inmediatamente se plantea una iniciativa aquí para exigir al gobierno que haga esos ceses

de toda la comisión mantener una tensión mediática que eso sí es un interés de partido porque no tiene otra forma

esa tensión esa presencia mediática en cualquier caso

solo decirle que creo que tiene una fijación

que el grupo socialista no ha querido incluir los nombres de los dos consejos que se citan en el dictamen el partido socialista nunca ha dicho que no quiera incluir ninguno en el dictamen

si hubieran estado hubieran estado no estaban incluidos no escribimos el dictamen

no estaban incluidos y lo que ocurrió con este dictamen es que lo votamos en su

en cualquier caso volver sobre ese asunto indica la impotencia en la línea argumental porque los nombres están

el dictamen y por eso se pueden utilizar luego no hay causa la cuestión no es eso sino qué se hace

y lo que ocurre es que ese dictamen está ahora dirigido
al gobierno que es quien tiene que actuar y nada más gracias eskerrik asko

de todo este debate lo que se está viendo es lo que ya hemos venido

parece que si no aparecen determinados nombres no existan responsabilidades políticas y volvemos a repetirlo nosotros nosotras creemos que si existen responsabilidades políticas

desde que se realizó la comisión de investigación lo dijimos después lo seguiremos diciendo lo hemos puesto así en nuestra enmienda a la totalidad que le hemos presentado al señor maneiro ya que

se deban a fijar sobre las personas que están actualmente ocupando sino lo que hay que cerrar es la puerta para que las personas que también tuvieron responsabilidades políticas en este caso puedan abrirla de nuevo

a trabajar en las instituciones públicas cuando sus responsabilidad política fue lo que llevo a la pérdida de millónes de euros este debate aportar sí que aporta señor carmelo barrio aporta y mucho el problema es que en esa comisión de investigación

pudiese salir dicho dictamen y nosotros no participamos por lo menos en ese acuerdo es que no apareciesen los nombre en las conclusiones ahí está el problema

pero porque usted lo que intentó a través de ese acuerdo es que en este caso y no es por tener fijación sino es por contar la verdad el partido socialista de euskadi pudiese votar

usted se fija continuamente en quitarse la responsabilidad política del rango hipotecario y viene aquí siempre a contarnos que si el rango hipotecario que si el rango hipotecario

como la primera porque ese dinero se pierde y ahora la administración pública tiene que pagar por unos edificios y por un túnel del viento

actual ni posiblemente la tendrá en el futuro con lo cual ese dinero lo seguimos pagando

continuistas en este caso pero usted por eso viene a defender cual fue la acción de su gobierno una y otra vez y en evitar las responsabilidades porque si sitúa la responsabilidad en el partido nacionalista vasco posiblemente alguna ustedes y ese es el mayor de los problemas que vamos a salir hoy de aquí habiendo perdido una de las votaciones más importantes que es cómo cerrar

porque señor maneiro usted lo presenta sabiendo que solo tiene un voto pero es que no cuenta con nadie más no cuenta con absolutamente nadie más usted ha hablado con el partido socialista de euskadi usted ya sabia la contestación no porque no van a poner nombres y apellidos

la sabíamos la sabíamos todos usted tampoco ha hablado conmigo tampoco ha hablado y usted es incapaz de votar nuestras iniciativas nunca vota nuestras iniciativas con lo cual

hablar con el partido socialista de euskadi meter las personas que usted consideraba que tenían responsabilidad política y en ese caso para facilitarle todos sus problemas porque el único que tiene problemas aquí para votar las iniciativas que son

es usted y son todo no puede votar nada que venga de euskal herria bildu con lo cual haga el trabajo inverso por lo menos se le pide eso y esa es su irresponsabilidad política de hoy y eso es traer una iniciativa para perder y eso es traer una iniciativa

en la que a la sociedad lo que le va a quedar claro es que aquí ni se asumen las responsabilidades políticas porque unos no ponen nombres y apellidos y otros traen las iniciativas para perder y al final lo que le queda a la sociedad es que las responsabilidades políticas no existen y en casos

el problema de todo esto qué es que no va a pasar absolutamente nada hasta que por lo menos la fiscalía porque sí que quiero pensar que una vez que la fiscalía actúe y pueden llegar a imputar incluso a algunas personas el manido código ético

eso sí me gustaría llegar a pensar y que el pnv se compromete por lo menos a ello que en caso de que estas personas sean imputadas inmediatamente dejarán sus puestos en el gobierno

ante todos o para todos es un gran error político y es un error político en el que se han puesto los intereses privados por encima de los intereses de la ciudadanía y ese es

un error se ha equivocado se ha equivocado usted de media a media en relación con el planteamiento

un grupo parlamentario de un parlamentario en relación con las iniciativas que presenta pues nos reafirma

usted se ha equivocado en la moción y se ha equivocado sobre todo en la estrategia este análisis o esta cuestión ya estaba debatido ya estaba aprobado había una punción y nosotros

empezó cumpliéndola haciendo una interpelación y bueno conociendo alguna de las

conclusiones de una comisión de investigación quedan dos años de legislatura y es mucho tiempo para ver cómo el gobierno

los fiascos de epsilon e hiriko y ante lo declarado por esta comisión de investigación y si no tendremos oportunidad

y además tiene usted señor maneiro mucha manía de hablar por los demás

somos o decir lo que es el ppy y lo que va hacer el pp y los condicionantes del partido popular los condicionantes del partido socialista

la isla democrática de este parlamento señor maneiro

le falta alguna asignatura en este juego parlamentario de reconocer que hay que actuar con inteligencia con estrategia en algunos momentos de reconocer el trabajo que se hace de no tratar de machacarlo después de enturbiarlo en beneficio propio yo creo que usted no ha conseguido hoy nada yo creo que no ha conseguido nada yo creo que algún representante anterior a mí ha dicho que esta iniciativa es un retroceso

esas claves de consejo que nos da a los demás hable usted por usted mismo cree pero no por nuestros posicionamientos políticos por cómo hay que hacer la política y por nuestras pretensiones lo que lamento es que usted no haya reconocido ese error

en lugar de con eficacia y a veces parece que usted disfruta

unas alegaciones efectivamente hubo una estrategia parlamentaria se hizo parlamentarismo se tomaron acuerdos por mayoría se votaron luego las alegaciones y cada uno en su sitio y cada uno respondió de sus votos así que yo creo señor maneiro que lo mejor que podía hacer es retirar esta

además enfadado de verdad no teatralmente enfadado

pero estando pasando lo que está pasando hoy por aquí todo menos nervioso porque

señor reyes la comisión es política y está formada por representantes políticos lo que no quita que lo

pese más la subjetividad que la objetividad que es lo que nosotros pensamos y defendemos y además hemos preguntado insistentemente

por qué no aparecen cosas en el dictamen que están en la documentación todavía estoy esperando a que me conteste no me ha contestado en todas las intervenciones que hemos tenido

y me parece bien pero su enmienda es ya

para que no puedan venir jamás es la primera vez que lo he visto pero bueno

si se cumple o se quiere cumplir lo que el señor arraiz dijo en su reunión con el lehendakari de que el animus pactandi este que está surgiendo

a un montón de cargos del gobierno incluso preventivamente hombre pues no sé si es la mejor manera de empezar pero bueno miren la

una pequeña maldad al principio se convierte al final en una gran perversión que es

en el fondo se ha intentado que ocurra porque en el fondo por cierto político una institución política en su ánimo de promover el turismo trasatlántico provoca una pérdida cierta de doscientos mil euros hay que cesar a alguien hay que pedir una responsabilidad

que se ha perdido en operaciones de riesgo para promocionar cosas lo tasamos es decir a partir de un millón a la calle si es menos bueno pues un cocorotazo cómo funciona porque yo recuerdo hace muchísimos años en un curso

un director general de una multinacional importante dijo miren en la toma de decisiones si uno toma cinco decisiones y acierta dos es mal gestor si acierta tres es buen gestor y si no toma ninguna decisión ni es gestor ni es nada el sistema que estamos provocando es animar

es la paralización de cualquier administración y le he enseñado antes todo lo que se decidió el famoso veintiocho de noviembre del dos mil siete y usted que es tan adalid de la verdad de la transparencia yo le voy a dar una idea no me lleve a la fiscalía para que usted la trabaje porque usted tiene mucho ánimo de llevar a la gente a la fiscalía conozco un parlamento que tiene un reglamento

donde por ejemplo a un solo parlamentario le dan tanto tiempo

me parece asimétrico incluso podría ser corruptela en su lenguaje entonces

los chiquitines tenemos desventaja para hablar al micrófono podrían

eso para que vaya viendo que hay asimetrías que permiten a gente tener mucha más representación de la que podría corresponder mire

dijo la frase anónimamente dijo que es difícil aceptar la verdad cuando las mentiras son exactamente lo que queríamos escuchar que es lo que puede estar pasando

si usted piensa que estamos nerviosos con usted pues a lo mejor en el pnv estamos todos tercados por el parlamentario de upyd pero creo que no incluso

que diga que somos amigos porque tanta insistencia

amildegian aurkitzen diren laurehun eta hogeita hamabost mila pertsonak o pago lo que me piden

con el permiso del señor tellería que no está presente intervengo nuevamente en este punto efectivamente eh bildu propone que este

de dos mil quince formule una propuesta de rechazo a las políticas de recortes

de decisión lo primero que tengo que decir es que que un gobierno tenga autonomía política o determinadas competencias

y esto vale para todos los gobiernos e incluso vale también para este gobierno vasco de hecho es algo que

recortes y tomar determinadas decisiones que no comparte

en el uso de sus competencias puede tomar decisiones claramente equivocadas y puede abogar por impulsar recortes sociales en contra de una mayoría de los ciudadanos

y este gobierno así lo ha hecho ha impulsado también

no garantiza automáticamente que se vayan a tomar las decisiones apropiadas ni que vayamos a tener mejor bienestar dependerá en última instancia del uso que hagamos

es más en muchos asuntos es mucho mejor pertenecer a una comunidad política más amplia y también en muchos asuntos suele ser apropiado y recomendable trasladar

a órganos o a gobiernos o a instituciones digamos superiores bien sea al gobierno de españa o a europa eh bildu propone efectivamente lo que propone en su moción y a partir de ahí y

eh bildu apenas propone ninguna medida concreta más allá de criticar algunos de los recortes sociales que se han impulsado o los recortes sociales que se han impulsado y más allá de exigir cambios en la fiscalidad que por otro lado ya se reformó hace aproximadamente un año

contra el fraude fiscal posiblemente estos asuntos sean imprescindibles porque la fiscalidad puede perfeccionarse y desde luego hay mucho que hacer en la lucha contra el fraude pero me da la sensación

para lograr el objetivo de destinar los recursos públicos a lo realmente importante y efectivamente lo importante son los ciudadanos atender los problemas reales de los ciudadanos pero yo creo que con lo que propone eh bildu pues no se solucionan

por su parte el lehendakari en aquella interpelación lo cierto es que tampoco dijo gran cosa más allá de negar que se hayan producido recortes como todos los gobiernos de todo el mundo

y eso sí también como todos los gobiernos reclamar estabilidad institucional y acuerdos entre todos los partidos políticos muy insuficiente en nuestra opinión no basta con prometer que no habrá recortes sociales ni con exigir

en el futuro ni desde luego reclamar acuerdos y estabilidad institucional en nuestra opinión deben tomarse determinadas decisiones para garantizar el estado del bienestar

mejorar la vida de los ciudadanos especialmente de los ciudadanos que peor lo están pasando como consecuencia de la crisis económica se trata por lo tanto de cambiar las políticas

el gobierno de españa y también las que está impulsando el gobierno vasco no basta con decir que no hay que impulsar recortes hay que proponer algo alternativo

ni decir que hay que luchar más contra el fraude fiscal no es suficiente hay que proponer más cosas nosotros hemos defendido las alternativas

reiterado en innumerables ocasiones en distintos debates pensamos que hay que reformar el estado autonómico

pensamos que hay que tomar decisiones relativas a la fusión de municipios pensamos que hay que reducir el sector público societario pensamos que hay que acabar con el gasto

la fiscalidad pensamos también que hay que luchar mucho más contra el fraude fiscal y desde luego hay que acabar también con todas las corruptelas con todas corrupciones

en este gobierno y desde el gobierno de españa con el objetivo ya digo de

lo importante nosotros por lo tanto puesto que en los últimos tiempos se habla mucho de acuerdos y de estabilidad y de

a llevar a cabo todo esto o apoyar que se haga o apoyar a quien pretenda llevarla a cabo porque consideramos que son medidas indispensables para atender mejor los problemas reales

lo que no vamos a hacer en ningún caso es participar en amplios acuerdos o grandes consensos para blindar el status quo vigente

que el lehendakari viva más tranquilo para eso nosotros acuerdos no vamos a firmar ninguno para proponer cambios y reformas profundas y radicales sí

no y ahí está nuestra enmienda que plantea lo que en nuestra opinión debería hacerse para acabar con los recortes sociales

nos encontramos y ya de paso cumplir el objetivo de déficit y por eso instamos al gobierno vasco a que renuncie a impulsar nuevos recortes sociales fortalezca el estado del bienestar

el sistema vasco de protección social impulse políticas eficaces que hagan frente al incremento de la desigualdad

y la pobreza impulse inversiones verdaderamente productivas y fomente políticas para la creación de empleo estable digno y de calidad y

lo que debe hacerse es modernizar el entramado institucional vasco

perfeccionar y armonizar el sistema fiscal luchar más y mejor contra el fraude fiscal acabar con el gasto superfluo de un entramado institucional sobredimensionado reducir el voluminoso sector público societario y de esa forma destinar los recursos públicos

esto es lo que dice nuestra enmienda pensamos que haciendo todo esto podríamos no solamente salvaguardar sino incluso fortalecer el estado del bienestar y además

e incrementar determinadas partidas presupuestarias que en los últimos años pues se han reducido y que consideramos que son fundamentales

ahora y en el futuro e incluso haciendo todo esto podríamos cumplir también el objetivo de déficit que es la excusa que algunos ponen para seguir abogando por los recortes en definitiva esta es nuestra enmienda

concreta mucho más que eh bildu en relación a qué es exactamente lo que proponemos marcamos una serie de objetivos y décimos qué es en nuestra opinión

debería hacer para alcanzar esos objetivos de defensa del estado del bienestar fin de los recortes rescatar a los ciudadanos de la crisis salir fortalecidos de la crisis económica en la que nos encontramos e incluso poder también cumplir el objetivo de déficit

eta zintzoa izan zure galderari erantzunez lo primero decir la verdad

sin olvidar las consecuencias derivadas de la falta de soberanía económica que restringen aún más las posibilidades de articular una política presupuestaria acorde con las necesidades de nuestro territorio

las exigencias de estabilidad presupuestaria impuestas desde el estado español como al gobierno vasco son dos elementos que limitan claramente los recursos disponibles como al gobierno vasco sailburu berdin berdin eta betetzeak

y los presupuestos futuros seguirán en la línea de conseguir una mayor eficiencia en el gasto público gastar menos

gastar menos eta beste gauza bat esaten dena zorpetzeari dagokionez el recurso limitado al endeudamiento el presupuesto de la diputación foral de gipuzkoa acudirá al nuevo endeudamiento por importe de setenta y cuatro coma diez millónes de euros y amortizara cuánto

setenta y cuatro coma setenta y seis millónes de euros zorpetzera jo barik jaurlaritzak egiten duen bezala ezta sailburu esto es lo que hay y esto es lo que hay para todos para todos los que estamos gestionando

el lehendakari se comprometió a mantener lo consignado en el dos mil catorce como se recoge

muchas gracias señora presidenta yo tengo que reconocer que cuando leí la moción no sabía exactamente

que se presenta pues se nos pide que el gobierno en la ley de presupuestos formule una propuesta de rechazo a políticas de recortes

no formulan esas cosas en las que se recojan las bases para la construcción de nuestro marco propio de decisión esto ya me suena más pero bueno yo

a ver exactamente por dónde iba la moción por dónde iba la propuesta o qué era realmente lo que se proponía y al principio pensaba que iba por el dinero de los ciudadanos y los presupuestos y el proponente nos decía si los presupuestos son de los ciudadanos o de las finanzas

son las finanzas de los ciudadanos lo que se aprueba aquí y cómo se gestiona el dinero de los ciudadanos no es una cosa contraria a la otra y luego se nos dice si estamos a las órdenes de bruselas o no estamos a las órdenes de bruselas pues bueno si se quiere estar en la unión europea

entonces o se está o no se está si se está hay que cumplir la normativa que viene de bruselas y si no se quiere estar lo que hay que plantear es que no se quiere estar

al cortejo previo al pacto de los presupuestos lo que no me ha quedado claro es porque esto

pero no venían aquí al parlamento a decir bueno nosotros estamos de acuerdo queremos pactar pero no queremos pactar pero no me ha quedado claro si ustedes quieren pactar o no quieren pactar si están dispuestos a pactar o no quieren pactar con estos señores me ha quedado claro que estos señores dicen que coinciden con ustedes al setenta por ciento ya

entonces quizá lo más interesante de este punto ya que lo que nos han traído son

respuestas de estos señores a su propuesta de pacto

yo evidentemente le diré que nosotros esperaremos a ver cuál es la propuesta de presupuestos del gobierno vasco

pues estaremos en contra y estaremos en contra porque que el

de presupuestos dotando del mismo gasto social que hemos tenido este año cuando ha consistido básicamente en recortes a las familias con hijos o a la conciliación de la vida familiar pues no va a contar con nuestro apoyo si el planteamiento que el partido nacionalista nos está haciendo eso yo ya aquí desde ahora

hacer escarceos de vamos a ver si pactamos o no pactamos o qué pactamos ahora si el punto que nos han traído

no sé si calificar de iniciativa rara o de iniciativa que invita a la perplejidad o cómo hacer lo que nos plantea hoy el señor

porque yo creo que se pretende escenificar en esta cámara una relación bilateral que

al partido nacionalista vasco y a bildu al gobierno vasco y a bildu pero no necesariamente se tiene que hacer un debate abierto es una iniciativa que no conduce a ningún sitio y que parte de un debate que fue el de política general en el que

aunque no lo hiciera con contenido pero sí en las formas y en la que también algunos grupos entre otros bildu le hizo guiños al lehendakari y le dijo el señor arraiz el portavoz de bildu le dijo al lehendakari en aquel debate de política general que estaba abierto a la negociación de los presupuestos

en la que bildu sabrá lo que quiere hacer el lehendakari sabrá también lo que quiere hacer pero que no es exactamente una competencia del resto de los grupos porque

ha habido un encuentro en una ronda de partidos que hizo también el lehendakari donde también manifestó muy buena disposición bildu donde además el lehendakari se esforzó por hacer un planteamiento de carácter como muy social también ha habido en este transcurso de tiempo una interpelación en la que el lehendakari volvió a repetir a bildu que le encontraba muy sincero en esta disposición de negociar pero que ya y yo entiendo que en estos momentos puede haber una cierta incomodidad de bildu que igual están llevando demasiado a un escenario o a un lugar que no quiere transitar y por eso bueno pues pretende salirse y entonces nos trae esta

es una iniciativa que cuesta poco leerla porque es muy corta pero cuesta mucho entenderla porque no dice absolutamente nada y además mezcla

a la interpretación propia o incluso a la especulación sumados lo que quieren decir y que están muy en la órbita del nacionalismo radical pero que para nada van a formar parte de un encuentro con otras fuerzas políticas si la

que plantea bildu me resulta rara o me resulta que invita a la perplejidad bueno ya el papelón de

porque trata de llenar de contenido de hacer de interprete de bildu algo que está en las antípodas además de sus intenciones porque hoy mismo hemos empezado este pleno por su cabezonería perdiendo una votación y además para algo que ustedes planteaban pero como no pueden votar con ellos no pueden votar con ellos se arriesgan a perder votaciones incluso contrarias a lo que piensan y ahora hace de interprete de bildu de lo que podía querer decir

lo que plantea el partido nacionalista vasco que también no sé como ha entrado al trapo y de esta manera tampoco tiene mucho sentido porque plantea que hay que mantener el gasto social

a no ser que todavía no se haya enterado o que no escuche los debates de esta cámara donde ha habido numerosas iniciativas hay un inconformismo de muchos grupos desde luego del mío

habiendo recursos porque hay partidos que son insuficientes habiendo recursos porque se han hecho políticas presupuestarias

obviamente esa enmienda es una enmienda que produce también una insatisfacción pero que en cualquier caso además tampoco tiene lógica no tiene lógica la

yo creo que ustedes si quieren tener relaciones o no háganlo

de esa posibilidad de una relación bilateral entre bildu y el partido nacionalista vasco

pues ya veremos cómo se confeccionan ya veremos qué proyecto de presupuestos trae el gobierno en principio efectivamente el gobierno tendrá intención de que

sea un capítulo restringido ya lo ha anunciado esa es la intención que ha llevado al consejo vasco de finanzas

en gipuzkoa nosotros ya anunciamos que no vamos a estar de acuerdo con una política de ingresos en la que por ejemplo después del esfuerzo que ha hecho este parlamento

de grupos políticos para sumar una mayoría de parlamentarios y de representantes institucionales para que haya una lucha eficaz contra el fraude fiscal en los ingresos no se planteen objetivos

hay otras instituciones entre otras la del estado que cuando se plantea los ingresos

hacer los presupuestos del ejercicio correspondiente sitúa una cantidad que está relacionada con los objetivos de la lucha contra el fraude fiscal porque para qué queremos tener

si luego no vamos a situar objetivos en el capítulo de los ingresos pero hay más cosas el objetivo del déficit es un objetivo que también tiene para debatir lo hemos debatido aquí en más de una ocasión la postura del partido nacionalista vasco y del gobierno vasco es la de asumir a rajatabla

que se tenga que aceptar un objetivo del déficit que viene de europa que luego españa coge de ese objetivo del déficit para el gobierno de españa la parte que quiere y por tanto se deja un déficit amplio

con las comunidades autónomas o a las instituciones locales les dice que cero hombre es primero una forma muy caprichosa de administrar

competencias que llegan a noventa y cuatro por ciento del presupuesto de los ingresos

que otras comunidades autónomas parece bastante ilógico pero es que encima luego tanto el estado como la mayoría de comunidades autónomas

en españa o en las comunidades autónomas o en el país vasco pero es que

imponen ese objetivo de déficit por ejemplo alemania al mismo tiempo

luego resulta que cambia sus variables económicas y que por ejemplo plantea un crecimiento para el año que viene con una reducción considerable

cómo es posible que en europa se fije un déficit público y en españa y en todos los sitios y luego se modifiquen el resto de variables económicas

con ese objetivo de déficit como es el crecimiento por ejemplo es clave para poder seguir en una senda

de enfrentarse a los efectos de la crisis económica bueno pues de todo esto vamos a tener que hablar y de todo esto me da la impresión de que no vamos a tener

yo creo que de entrada nosotros vamos a tener serias divergencias con el partido nacionalista vasco y con el gobierno vasco pero ya veremos también bildu qué hace porque una cosa es predicar y otra es dar trigo aquí plantea unas cosas pero luego en las instituciones que gobierna

veremos también cuáles son las intenciones del gobierno en su proyecto de presupuestos sabemos cómo inició la legislatura y los antecedentes son bastante malos fue esta cámara la que le corrigió con su planteamiento de oposición a la política de recortes en el presupuesto de dos mil trece la que llevó después a los presupuestos del dos mil catorce pero todos sabemos que la intención del gobierno vasco en un inicio

su capacidad de gasto y tocaba todo lo que hoy dice en la enmienda la señora gorospe que hay que mantener

todo lo rebajaba y hubo que corregirlo después en una política presupuestaria distinta después de haber tumbado esos presupuestos del año dos mil trece

las cosas abiertas todavía no sabemos qué es lo que va a presentar

que va haber divergencias profundas y divergencias notables en lo que puede ser la intención de política presupuestaria de política social y de política de servicios públicos del gobierno vasco y la que podamos tener los socialistas ahora hagamos ese debate cuando toque cuando corresponda y mientras tanto si el señor urruzuno no tiene un problema de relación con el gobierno vasco

si le lleva demasiado de la cuerda si le parece que esa relación

pero no necesariamente en una cámara en la que no hay ningún contenido político en lo que usted plantea sino

no sé sabe muy bien el qué por lo tanto es evidente que no van a contar

y es evidente que no van a contar con nuestro apoyo para esas enmiendas que unas son del

la otra la suya ya es que está superada por una realidad socio económica

sí gracias presidenta no únicamente para responderle al señor prieto que

efectivamente eh bildu ha presentado una moción que dice lo que dice

pero que parece que plantea un debate en relación a los próximos presupuestos y yo podría haber hecho lo de usted o podía haber bajado a la tribuna

qué es lo que upyd defiende en relación a las medidas que deben tomarse de aquí a las próximas semanas y cuanto antes y también las medidas que deben en esos presupuestos yo he querido por lo tanto entrar a ese debate y explicar no la moción de eh bildu que ya digo que dice lo que dice y es muy poco y lo he explicado sino nuestra enmienda y nuestra enmienda es lo suficientemente amplia y concreta como para que usted señor prieto

de analizarla y de explicar incluso qué es de esta enmienda de upyd

le gusta y qué es exactamente lo que no le gusta más allá de decir que he hecho de intérprete del grupo eh bildu yo creo que nuestra enmienda es muy clara marca una serie de

somos claros nosotros esto lo venimos defendiendo desde hace mucho tiempo y lo defendemos y lo proponemos en cerrado y en abierto y ayer mismo se lo plantee al lehendakari

si es que existe esa negociación presupuestaria y lo que hemos venido planteando también durante los últimos ejercicios nosotros queremos ser claros queremos explicar al parlamento que para eso está cuáles son nuestras medidas y qué es lo que proponemos para tratar de alcanzarlas esto es lo que nosotros hemos hecho

defienda las ideas del grupo socialista entre a debate no las posponga

y ustedes lleguen finalmente a un pacto presupuestario con el partido nacionalista vasco es la opción más probable para que de esa forma se mantenga su matrimonio de conveniencia que trata de salvaguardar los intereses de estos dos partidos políticos posiblemente

pues todavía no puede ir al fondo de la cuestión y al menos explicar cuáles son las propuestas del grupo socialista y en lo que a nosotros respecta

usted va a votar en contra de esta iniciativa o de esta enmienda de upyd ya digo ahí señalamos una serie de objetivos

una serie de medidas explíqueme por favor si usted quiere cuáles de estas medidas usted no comparte y si no las comparte pues dígalo y efectivamente vote en contra

de interprete del grupo eh bildu sabíamos de qué querían hablar querían hablar de los presupuestos han formulado la moción que han planteado con muy escaso recorrido muy poco concreta y seguramente muy mal planteada pero nuestra enmienda sin embargo pensamos que sí está bien planteada es concreta y sobre esa enmienda usted y el resto de los grupos también pueden posicionarse
yo pido el voto para esta enmienda de upyd a todos los grupos eskerrik asko maneiro jauna

enmienda porque hemos empezado diciendo que tanto el lehendakari

general y también en la respuesta a la interpelación del señor urruzuno dijo que lo primero decir la verdad lehenengo egia esan y partimos de eso por tanto el principio de prudencia

dirigiendo las actuaciones del gobierno de nuestro grupo parlamentario como grupo que da apoyo político al gobierno lo que pone en nuestra enmienda es un compromiso de partida

la cifra del presupuesto se concrete y como usted bien sabe el gobierno vasco está abierto a negociar con todos los partidos políticos que se ofrezcan a ello

apoyo y yo como voy a hacer otro esfuerzo para que no sea así permítame que le ilustre con unos datos

en el debate de política general que se desarrolló aquí hace menos de un mes euskadik estatuko

euskadi tiene el cinco por ciento de la población del estado sin embargo la renta de garantía de ingresos es el cuarenta por ciento del total del estado estoy haciendo una traducción simultánea

somos la única comunidad del estado donde se compensa a las

en relación con el copago farmacéutico que se aplicó desde madrid otro dato señor damborenea somos la única comunidad del estado que mantiene las ayudas a la conciliación la única que mantiene las ayudas por hijo o hija

ustedes gobiernan en otras comunidades autónomas y no las dan somos la única comunidad y usted está diciendo que garantizando que ese será el punto de salida que ojalá por disponer de recursos pueda mejorarse dice que con ese punto de salida que es mucho mucho mucho más

y un último dato hemos conocido que nos dio también el lehendakari

de la asociación de instituciones sociales que sitúa a euskadi como la comunidad que mejor está resistiendo a la crisis gracias al mantenimiento de las políticas sociales voy más rápido porque si no no me va a dar tiempo a poder responderles a todos y a usted también quisiera señor prieto dedicarle

lo primero decir la verdad se estima que los ingresos y que el gasto operativo será similar al del año pasado por eso nuestra enmienda y el discurso

y a partir de ahí podremos mejorar asumir a rajatabla el margen de déficit es que señor prieto cada vez que ustedes dicen esto a mí me entra no sé ganas de reírme ya no es sorpresa es otra cosa

señor erkoreka vuelva a recordarles por la puerta de atrás querían hacerlo por el procedimiento de lectura única de acuerdo con el partido popular y eso esa regla de oro que sacralizó el cumplimiento del déficit y que nos obliga a cumplir nos dice que no hay que llevarlo tan a rajatabla

tenía un objetivo de déficit del uno coma tres por ciento ochocientos cincuenta y seis millónes de euros y llegaron a duplicarlo casi dos coma cincuenta y seis por ciento mil seiscientos setenta y dos millónes con el beneplácito de zapatero bien es cierto que después de esto ustedes

para que esto no pudiera hacerse en relación con la reforma fiscal usted bien sabe porque conoce en profundidad la reforma fiscal que se ha cometido

se desplegará con toda su fuerza sobre todo sobre las rentas

podrán verse efectivamente en el dos mil quince a finales del primer semestre del dos mil quince urruzuno

lo que tienen que hacer el grupo nacionalista y bildu es cambiar de interlocutores porque a lo mejor se cargan el pacto del poco feeling de los que están hablando hoy aquí y no consiguen

el pacto este que sí están todos dispuestos a pactar pero no están dispuestos a pactar pero a ver cómo pactan y si están en el sesenta el treinta el setenta o el ochenta por ciento

para llegar a buen puerto en esas negociaciones que están ustedes teniendo señora gorospe lo primero decir la verdad

tenemos mucho gasto en bienestar social porque nos gastamos tropecientos millónes de euros en la renta de garantía de ingresos

porque el tema es si estamos gastando bien o mal entonces claro

que los errores de gestión eran de cincuenta millónes creo que ahora estamos ya en setenta millónes

eso está bien gastado eso es una buena gestión luego me dice lo del copago lo del copago este gobierno hay que reconocerle que es caradura porque claro este gobierno dice yo estoy en contra del copago

entonces para que los que menos rentas tienen no sufran y luego no les avisa nadie por si acaso alguien les reclama vamos a compensarles y el resto

más ingresos de los previstos en el presupuesto más ingresos para este gobierno porque si les parece tan mal y tan injusto devuélvanleel dinero a todo el mundo

vamos a decir la verdad de los temas y de las cosas y luego me habla de las ayudas a las familias con hijos y la conciliación pues vamos a decir la verdad

de ampliable eso qué significa que no se agota

hemos dicho la verdad cuando se aprobaron esos presupuestos está claro que no a la vista está resulta que ya no es ampliable y ahora no es ampliable por decreto del gobierno vasco

y no estamos hablando de tanto dinero porque por el copago el gobierno ingresa más del doble

de escasos diez millónes de euros el gobierno ingresa mucho más pero se lo gasta en otras cosas porque no estamos hablando de lo que los recortes que nosotros hemos denunciado de ayudas a la conciliación a las familias con hijos se han producido porque este gobierno de repente tiene menos dinero o menos ingresos del que estaba previsto no es cierto ha tenido más ingresos de los previstos ha dispuesto de más dinero

no el copago ya que lo ha citado usted el copago pero a la vista está que ha dispuesto de más dinero cuando

para el plan del euskera que estos señores también estaban de acuerdo cuatrocientos millónes de euros cuatrocientos ahora nueve millónes para las ayudas a la conciliación no ahí se recorta entonces digamos la verdad como usted decía pero digámosla toda y evidentemente como de su enmienda no se traduce la realidad de lo que ha ocurrido porque lo que ha ocurrido es que se han hecho recortes no previstos y que incluso la ley de presupuestos decía que eso no se podía recortar y a pesar de eso lo han incumplido porque es un mandato legal que esa partida es ampliable exactamente igual de ampliable que la rgi porque por eso viene

o exactamente igual de ampliable que las ayudas a las víctimas del terrorismo que por eso viene en otro punto exactamente igual de ampliable que todas las partidas que vienen en el anexo

ampliable y por lo tanto hay una cosa que es clara es decir cada grupo político

y evidentemente nunca nunca nadie dispone de todo el dinero que le gustaría nadie ningún gobierno ni siquiera

pero usted me reconocerá que cuando se habla aquí de la crisis económica y tal y viene el lehendakari a la tribuna y nos dice

pero luego están todo el día pidiéndole al gobierno de españa que invierta que invierta que invierta y cada vez más dónde está su coherencia

o qué pasa el gobierno de españa está más saneado que el gobierno vasco y por eso el gobierno de españa tiene que cumplir los

antes de tiempo incluso por eso le digo digamos la verdad

señor maneiro usted en esta segunda intervención refiriéndose a la iniciativa de bildu ha dicho lo siguiente que

demasiado y que la iniciativa parecía que decía por eso le he llamado interprete no se moleste claro si parecía que decía y usted ha tratado de darle

ha hecho de intérprete me extraña esa actitud porque en este mismo pleno hoy hemos perdido una votación con un planteamiento suyo por no querer votar con ellos y hombre que no quiera votar que no quiera coincidir en una votación

de interprete de bildu pues ciertamente es una contradicción importante señor

nos preguntaba usted qué diferencias hay entre el presupuesto entre el proyecto de presupuestos que tuvo que retirar el gobierno en el dos mil trece y el presupuesto del dos mil catorce bueno como veo que no las percibe

se las voy a explicar la primera tuvo que cambiar el gobierno los ingresos

para hacer los presupuestos del año dos mil trece y tuvo que cambiar los ingresos para hacer los presupuestos del año dos mil catorce y los tuvo que ampliar bastante varios cientos de millónes segunda tuvo que aceptar una reforma fiscal que es la que da más recursos para este año

para los años siguientes segunda que tuvo que aceptar segundo cambio tercera tuvo que aceptar en un acuerdo político

sobre el que tenemos diferencias sobre cómo se aplica pero lo tuvo que aceptar y cuarto tuvo que aceptar el mantenimiento de políticas públicas y de políticas sociales el proyecto del señor urkullu siendo candidato a lehendakari y después siendo lehendakari era recortar entre mil trescientos y mil cuatrocientos millónes el presupuesto del país

llevó importantes recortes tanto en sanidad como en educación como en políticas sociales y eso hubo que recomponer en el proyecto de presupuestos de dos mil catorce parece mentira

porque me ha estado escuchando luego ahora ya lo sabe y en relación con el partido nacionalista vasco vamos a ver señora gorospe todo a la vez no primero nos dice que cumplimos con el déficit a rajatabla y luego nos saca que en no sé qué año lo incumplimos

cuál es mi reflexión sobre el déficit para ver si también la van cogiendo no es lo mismo el déficit de hace dos años o de hace tres años o de hace cuatro años que el déficit actual el déficit se ha ido recortando se ha ido recortando curiosamente para el país vasco porque como usted sabe

cuando españa regula el déficit para el conjunto de las autonomías plantea diferentes déficit a las comunidades autónomas y no todas tenemos el mismo techo de déficit el país vasco el año pasado tenía el uno por ciento para el dos mil quince tendrá

pero hay otros márgenes aun habiendo otros márgenes para otras comunidades autónomas

las comunidades autónomas que tienen más margen se lo han saltado y se lo ha saltado el propio gobierno de españa y además han cambiado las variables económicas sobre todo las del crecimiento que hay en europa para el año que viene pero fíjese yo no lo he planteado para que no se vaya usted por donde no debe

el objetivo de déficit yo lo que le digo es que ustedes hagan autogobierno y que defiendan un acuerdo sobre objetivo de déficit que no acepten de pies juntillas lo que dice el gobierno de españa del cero coma siete por ciento

el cupo que unilateralmente ha doblado por segundo año en el proyecto de presupuesto para el dos mil quince el gobierno de españa

simplemente de las pérdidas de tiempo en las que se plantean muchas veces las relaciones bilaterales entre ustedes

entonces lo que les digo es defiendan el autogobierno defiéndanlo con fuerza con firmeza y digan que nosotros necesitamos un objetivo de déficit por ejemplo diferente mayor por qué entre otras razones porque teniendo el menor somos

de todas las comunidades autónomas luego tendremos más necesidad de gasto para atender a muchas más políticas públicas que hay que hacer eso es razonable o no es razonable lo entienden o no lo entienden están dispuestos a defenderlo o no están dispuestos a defenderlo en fin asuman su compromiso político es que están gobernando es que están al frente de este país

hay que defender el autogobierno hay que defender las competencias y el lehendakari tendría que estar a la defensa de un

déficit público y en la defensa de mayores inversiones y en la defensa de más capacidad de gasto y en la defensa de objetivos de lucha contra el fraude fiscal situados económicamente en los presupuestos y de todo esto está un poquito ausente está de muy buen rollito y por eso ahora tienen este problema con bildu que si confío en usted no confío quiero negociar no quiero negociar y por eso estamos ahora hoy aquí discutiendo porque

dejémonos de esas palabras que son bonitas y que en realidad no quieren decir nada y vayamos al fondo de la cuestión defienda este país

defiéndalo con sus capacidades y con sus competencias defiéndalo tratando de que tengamos un presupuesto en el año dos mil quince con más capacidad de gasto con más recursos y hay fuentes

para poder dotar a ese presupuesto de más recursos este es el objetivo o esto es a lo que están ustedes emplazados
no se envuelvan no se envuelvan en otras cosas eskerrik asko prieto jauna

goce del voto favorable de todos los grupos tal y como ha ocurrido en otros parlamentos autonómicos en los últimos tiempos han transcurrido ya ocho años desde la intervención judicial de las empresas

y afinsa y como consecuencia de ello el concurso necesario de la empresa

por esta situación es de casi medio millón y el importe

de euros el veinticuatro de junio de dos mil trece

de octubre de dos mil trece las cortes valencianas el treinta de octubre de dos mil trece la asamblea regional de murcia el seis de febrero de dos mil catorce la asamblea autonómica de ceuta y el trece de febrero de dos mil catorce el parlamento gallego

por unanimidad de todos los grupos iniciativas semejantes a la que hoy planteamos desde upyd y también desde el grupo socialista casi

el procedimiento de liquidación concursal se encuentra paralizado en la práctica siendo ineficaz ante un macroproceso de esta envergadura y con una coyuntura económica desfavorable detrás de ello se encuentra medio millón de personas más de

las familias esperando justicia de las cuales han fallecido por cierto un importante número debido a su elevada cada año perdido pesa como una losa para las familias que no pueden recuperar sus ahorros y más en un momento de especial necesidad como es la presente crisis

por ello urge que el estado apruebe cuanto antes una solución a este grave problema social los datos constatados por las administraciones concursales demuestran

afectados y su pertenencia a estratos sociales en su mayoría humildes que confiaron en esas empresas como cualquier ahorrador lo hacía con entidades financieras reconocidas el papel y la responsabilidad del estado es central en la búsqueda

urge resolver el problema de una manera beneficiosa para los ciudadanos y para la dignidad y credibilidad del estado dederecho a pesar del alcance social y económico del problema todavía no se han instrumentado medidas extraordinarias de respuesta a la situación en la que se encuentran numerosísimos consumidores que fueron presuntamente víctimas de unas actuaciones que están siendo objeto de investigación penal y la perspectiva es que la duración de los procedimientos judiciales en curso serán muy dilatada por loque es preciso y urgente encontrar una respuesta eficaz al problema planteado

afinsa que en su conjunto agrupa y defiende a más del cincuenta por ciento de las familias afectadas se ha planteado a las instituciones una fórmula de solución que daría

a la casi totalidad de las familias afectadas por la insolvencia de las empresas

la propuesta consiste en síntesis en que el ministerio de economía a través del ico dirija a quienes ostentan la condición de consumidores y usuarios una oferta

en los respectivos procedimientos concursales en curso de fórum y afinsa no se trata de una fórmula nueva y además no produce incremento del déficit público de ahí nuestra proposición no de ley para que este parlamento manifieste su apoyo y solidaridad con los pequeños ahorradores afectados

insta al gobierno vasco a que solicite al gobierno de españa lo siguiente por un lado

que les permita avanzar a la mayor brevedad posible hacia la finalización de los respectivos procedimientos judiciales y que valore detenidamente y si lo estima procedente acepte y lleve a cabo la propuesta planteada por la plataforma unitaria

una solución a los afectados como decía antes consistente el ministerio de economía a través del ico

de las cantidades reconocidas como crédito en los respectivos procedimientos concursales en curso estamos hablando de cuatrocientos setenta y siete mil familias afectadas en el conjunto del país

familias afectadas en euskadi estamos hablando de un importe del ahorro afectado que supera los seis mil millónes de euros y estamos hablando de que ocho años sin que se haya encontrado una solución justa a esta injusticia y a la situación en la que se encuentra miles y miles de ciudadanos

iniciativas idénticas se han aprobado en otros parlamentos autonómicos y se han aprobado de manera unánime sin embargo sigue sin producirse una respuesta clara y unánime por parte del gobierno

de fórum filatélico del engaño como quieran ustedes llamarlo ya existían asociaciones de consumidores que la armaron sobre este tipo inversiones se trata de que el gobierno impulse medidas concretas para mejorar la situación en la que se encuentran estas personas algo se ha hecho en el pasado pero lo cierto es que no ha tenido repercusión práctica en la práctica

a esta situación es por esto que hemos presentado esta iniciativa la iniciativa del grupo socialista es prácticamente idéntica a la del

iguales da igual que salga aprobada una o la otra son prácticamente idénticas yo por lo tanto

tanto para la una como para la otra y espero que además el voto sea unánime y podamos ayudar a solucionar

saludar a los representantes de la plataforma de afectados por este escándalo

como ya lo ha hecho el portavoz de upyd que

dos iniciativas son idénticas también la enmienda que se había presentado simplemente por técnica parlamentaria porque en realidad no son

sino que son propuestas que están realizadas las dos por

que así nos lo trasladaron en el mes de julio y que nosotros aceptamos traerla a este parlamento y pedir el pronunciamiento de este parlamento en un contexto político de parlamentos y de instituciones políticas en las que se está haciendo lo mismo ya se ha citado aquí

efectivamente hay un número importante de comunidades autónomas y de instituciones en este país que se están pronunciando de darle una solución definitiva a este asunto yo quisiera darle un enfoque a este problema

justo donde creo que está porque no se trata de hacer mucho la historia

salta hace ya más de ocho años que afecta a casi medio millón de familias

y el itinerario de este problema lo que yo creo que corresponde en este momento aquí es hacer una valoración de carácter político sobre qué podemos hacer qué podemos aportar y qué podemos enjuiciar en relación con esto que ha pasado

quisiera decir con toda la sinceridad es que ha fallado la política ha fallado la justicia y ha fallado la economía

donde la política tiene que intervenir tiene que intervenir la política porque si la justicia hubiera funcionado tendría que estar resuelto si la economía hubiera funcionado tendría que estar resuelto y cuando no funciona ni una cosa ni la otra y cuando se produce una estafa masiva

de los patrimonios de los ahorros y de la capacidad económica de las familias de este nivel donde fundamentalmente son familias con recursos escasos que

o que no haya una respuesta cuando menos prudente en el tiempo no deja de ser un elemento de profunda indefensión de aquellas personas que sufren situaciones de este tipo y por lo tanto este es un problema político y hay que arreglarlo desde la política hay que darle el impulso desde la política en lo económico y también en la justicia porque además si fuéramos capaces de darle ese impulso y de resolver

estaríamos también dando un impulso y una solución a problemas similares que puede suceder o a prevenir problemas de este tipo que pudieran suceder en el futuro

no es una acción de gracia la que se hace hoy en este parlamento con este debate como no es una acción de gracia la que se ha hecho en los demás parlamentos

nosotros como grupo socialista asumimos la responsabilidad de no haber sido más eficaces y de no haber podido dar una solución mayor mejor a este problema a lo largo de todo este tiempo

para lo que se están jugando esas familias que hay muchas familias

porque han fallecido porque en este tiempo muchas de estas personas por razones lógicas naturales de la vida

hay una deuda y hay un problema tan grave que es urgente el que hagamos

es un problema fundamentalmente político aunque tenga una vertiente económica

una vertiente de justicia porque es un problema de raíz social porque es un problema en el que hay una situación de desfachatez tremenda sobre cómo se hacen algunas operaciones económicas

como estas es por lo que este parlamento tiene que tomar una posición y es por lo que el grupo socialista hemos traído aquí esta iniciativa

presentado primero upyd y por lo tanto votaremos en consecuencia y pedimos a todos los grupos que más allá de entrar en responsabilidades que si alguien quiere entramos más allá de entrar en rifirrafes que si alguien quiere entramos pero no es nuestra posición estamos en una posición absolutamente constructiva ahora si alguien quiere

pero en fin no estamos en esa fase decía y por lo tanto lo que pido es que sobre esto tengamos una posición política común y desde luego nosotros estamos absolutamente convencidos de la justicia y de la necesidad de hacer esta iniciativa y de que este parlamento se produce a favor

muchas gracias señora presidenta hombre como no podía ser de otra

el grupo popular tiene que votar a favor de esta iniciativa porque es la misma que el grupo popular presentó en el parlamento de canarias

bienvenidos sean al club los que ahora nos traen aquí iniciativas del partido popular en otros parlamentos europeos

y por lo tanto digo y repito vamos a votar a favor como no podía ser

en lo que se pide a la hora de transcribir literalmente lo que el partido popular planteó en el parlamento de canarias como decía pero yo creo que

si ahora todos reconocemos el problema que hay a la hora de dar soluciones habrá que plantearse por qué tenemos este problema hoy

esto de que haya fallado todo ha fallado la justicia la economía la política

estamos hoy con este tema y hay unos afectados porque en su momento hubo un gobierno por cierto del partido socialista

una decisión y adoptó unas medidas como todos los gobiernos adoptan decisiones y medidas con bancos y otras entidades lo que ocurre es que en esos otros casos además de la medida de la intervención

y en este caso no se hizo y no se hizo además incumpliendo una ley que preveía que había que crear un fondo para eso

y efectivamente ahora estamos en la fase que estamos y ha fallado la justicia

qué instrucciones dio a los abogados del estado y a los fiscales para que el enredo jurídico que existe hoy sea el que es claro

lo han puesto muy complicado lo han dejado muy complicado porque no es lo mismo decir ahora aquí venimos todos queremos solucionar este problema

todos somos culpables de todos ha fallado todo claro todo todo

ya dijimos desde el principio que eso estaba mal hecho y que eso no había que hacerlo así por lo tanto repito y reitero como no puede ser de otra forma y de otra manera nosotros vamos a votar a favor de la propuesta que se plantea que es la misma que presentó el partido popular en canarias

lo cual no implica señor prieto y si quiere lo hablamos que evidentemente

queriendo o no y a instancias de quién se produjo esa intervención porque curiosamente a diferencia también de otras intervenciones aquí nadie sabía que había un problema de hecho nadie había denunciado ni demandado un problema en ningún sitio

se produjo un problema y lo produjo un gobierno y a lo mejor había un problema que había que solucionar pero usted me reconocerá que visto cómo estamos ocho años después no fue la mejor actuación
del gobierno del señor zapatero eskerrik asko damborenea jauna